sailburua señor itxaso como se ha dicho y reiterado desde este departamento lanbide

desde este departamento en general pero desde luego desde lanbide en particular tenemos como objetivo principal en el ámbito del empleo la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras y la

no obstante la labor de lanbide no es la de impartir esa formación ni la de mantener centros propios de formación profesional

y contratar las mejores proveedores de formación los especialistas en contenidos y en metodologías de aprendizajes que garanticen los mejores

siempre por el mantenimiento de una red de formación profesional potente y bien conformada y esos centros a los que usted hace referencia lo son dentro de esa red

integrados de formación profesional tanto los públicos como los privados son esos centros los que están perfectamente dotados para hacer las funciones del centro de referencia en euskadi no necesita por tanto lanbide

no lo ha hecho porque ya hay centros integrados red para ello muchos de los cuales pertenecientes a una de las familias profesionales con más amplia implantación en el tejido productivo vasco como es el de la fabricación mecánica su no homologación como centro de referencia no ha tenido

los ciudadanos de sestao y lasarte porque este gobierno no les ha abandonado sino

adscribirlos al departamento de educación política lingüística y cultura

señor consejero pero es cierto que el departamento de educación hace más de un año

si hace algo o deja de hacer algo con estos centros el departamento de educación no ha asumido formalmente esa competencia y por otro lado déjeme decirle que el día pasado en la comisión hablábamos y conveníamos además que las políticas activas de empleo por sí mismo

suficientemente capaces para generar empleo pero convendrá con nosotros en que hay políticas activas más eficientes unas que otras estamos hablando de localidades como sestao por ejemplo con una tasa de paro la más alta de euskadi

una de cuyas causas es la baja cualificación nosotros tenemos un número importante de jóvenes

un índice muy alto de personas ocupadas con una sobrecualificación es decir que hay sobrecualificación

que se emplean muchas veces esta situación da lugar a que la formación ocupacional tenga un papel muy importante estos centros han renunciado se ha renunciado desde el gobierno vasco a que sean centros de referencia a nivel de españa tenían esa mención y se ha renunciado a ello el departamento de educación por otra parte no sabe no contesta no responde con la

primer momento no creo que se vayan a disipar las incertidumbres y la preocupación de estos municipios donde al menos en uno de ellos ya ha habido un pronunciamiento en el ámbito municipal instándole al gobierno a que no proceda a ese cierre

me ha parecido bastante inquietante su respuesta acerca de que el servicio público de empleo solo planifica

gran cosa residenciado en estos centros

entendemos que se está produciendo un abandono de lo que han sido sus funciones hasta el momento muy importantes y la respuesta que

parece que va en la dirección de lo que algunas personas plantean y es que estamos hablando de una externalización abierta pura y dura por no hablar de privatización de esos programas y servicios han planteado en el ámbito municipal crear

y el ayuntamiento en esos centros a la hora de conocer las necesidades formativas que puede tener la actividad económica las empresas y que necesitan las personas desempleadas que quieran incorporarse al mercado laboral e incluso aquellas personas que estando ocupadas quieren mejorar sus competencias

lamento que no lo haya hecho en forma de interpelación sino de pregunta porque

porque nosotros vamos a resistir ese planteamiento que usted hace entendemos

sabemos muy bien en este gobierno que sestao tiene grandes tasas de paro y estamos haciendo esfuerzos

desde el empleo desde la vivienda y desde las políticas sociales por lo menos desde mi departamento

no sé si no me ha entendido o no me ha querido entender pero lanbide planifica pero lanbide contrata los mejores centros que encuentra en el país para impartir formación y por lo tanto

en ese sentido la actividad como centros de formación para el empleo cesó en dos mil nueve en el centro de lasarte cierto pero en julio de dos mil trece

también cesó en sestao cuatro años más tarde a pesar de que en dos mil catorce se dio un curso de neumático en el año dos mil catorce se hizo la adscripción

y durante este año dos mil quince es intención de este departamento ocupar las instalaciones e implementar las líneas educativas de formación profesional que se consideren las más idóneas para esos centros con respecto a la plantilla de los centros

es verdad que no ha podido ser transferida al departamento de educación y eso ha retrasado ciertamente

la planificación pero lo hemos hecho precisamente para preservar esos puestos de trabajo porque hay desfases de conocimiento del profesorado transferido

diversos puestos en centros con ciclos formativos según los criterios del departamento de educación y hay también falta de conocimiento de euskera

no es una evaluación con consecuencias académicas es una evaluación que se realiza internamente en el centro

y que persigue la obtención de información para la mejora del sistema la normativa básica nos obliga a llevarla a cabo

y permite una intervención efectiva del ejecutivo autónomo en el ejercicio de sus competencias este gobierno lo utilizará en beneficio de la calidad de la enseñanza y de nuestro alumnado

otra cosa es lo que pretende hacer el gobierno central con las evaluaciones de fin de etapa esta misma semana como he dicho hemos manifestado nuestro más profundo rechazo ante el proyecto de real decreto que regula las pruebas de evaluación final

se trata de una clara invasión competencial y por ello hemos solicitado la retirada de dicho proyecto de real decreto beraz eta momentuz beste ebaluazioak alde batera utzita

beti ere ezaugarri horiek adinari eta ikasle horien baldintzei moldatuz de este modo abordamos la evaluación de tercero de educación primaria

y la evaluación diagnóstica el segundo proyecto del plan como ya he mencionado

de currículo de la educación básica y de sus correspondientes anexos en los que venimos trabajando desde hace tiempo con la participación activa de los agentes educativos

hemos propuesto la división de la educación primaria en dos ciclos primero segundo y tercer

y cuarto quinto y sexto cursos por otro en consecuencia la evaluación de tercero de primaria es totalmente coherente con el modelo educativo pedagógico impulsado dentro del plan heziberri dos mil veinte

que venimos desarrollando desde dos mil nueve y que durante este curso abordará su quinta edición

también en las pruebas de tercer curso de educación primaria teniendo en cuenta que esta es además la primera ocasión en la que evaluamos este nivel

sin previamente disponer del correspondiente currículo y un cuidadoso pilotaje de las pruebas de los soportes y de las condiciones y características de este proceso de evaluación

un año menos que quienes realizan actualmente la evaluación diagnóstica por ello resulta imprescindible efectuar la correspondiente adaptación a la edad del alumnado objeto de la prueba en consecuencia

sobre el desarrollo de este pilotaje de este modo durante el curso dos mil catorce dos mil quince se llevará a cabo

que se realizará durante el mes de mayo en un total de treinta centros y en cada centro en dos grupos

estatu mailan confederación de padres y madres de alumnos y alumnas de la escuela pública proposamen berdina

esta prueba contará con las siguientes características pilotaje en treinta centros

en cinco competencias competencia en comunicación lingüística en castellano en comunicación lingüística en euskera

matemática y científica para nosotros es un aspecto muy importante que este gobierno plantee las evaluaciones como un instrumento que debe ser para la mejora y para medir todas las competencias y es por ello que estamos utilizando evaluación diagnóstica simplemente primero una prueba piloto para adecuarla y después ver exactamente cómo se debe hacer pero siempre con el mismo objetivo mejorar el sistema de educación y no creo que sea nada nuevo porque la evaluación diagnóstica se viene haciendo y ahí nadie se ha planteado nada en contra y ahora sí si hay un pequeño cambio parece que sí

con unas revalidas que está planteando el ministerio aquí como he dicho las evaluaciones finales que pretende imponernos el gobierno central invaden claramente las competencias autonómicas y en materia educativa con un objetivo centralizado y excluyente y reducen el papel de esta zalamera vigilancia

y excluyente la fijación de los contenidos de las materias de los y las profesionales de educación que deben impartir cuando se trata de una materia que requiere la participación de los gobiernos autonómicos y además es madrid quien regula las pruebas de evaluación externa del alumnado final de eso y bachillerato mientras que euskadi queda relegada a mera ejecutora de los criterios

esto es de lo que estamos hablando y esto es de lo que estamos todos en contra y usted lo está mezclando

con las medidas que intentamos poner para mejorar nuestro sistema y todo con el

gracias señora presidenta buenos días a todos bien cuando se presentó la estructura la nueva estructura del departamento y el plan

que por cierto se presentó antes a los medios de comunicación que a este parlamento a los propios interesados se señaló que el modelo se basaba

y que los valores debían de ser la cercanía la confianza el compromiso el equipo y la evolución

los tenía desde hace mucho tiempo pero bueno en fin de lo que se trataba yo creo y lo dijimos en ese momento era que el plan sirviese para el cumplir el objetivo de servir a la seguridad

se puso este grupo puso de manifiesto en aquel momento que era bueno

mejorar la atención y la seguridad ciudadana la investigación la inteligencia policial la prevención y la protección era bueno pero estos objetivos no se han conseguido las formas de proceder se pueden perfeccionar yo puedo estar de acuerdo con ello se pueden cambiar pero siempre que esos cambios sean para mejorar y se mejora siempre desde el consenso

para introducir cambios se debiera tener en cuenta la opinión y la aportación de los agentes de base

porque de esa manera su implicación seria mayor pero eso no ha sido posible no se recogieron aportaciones incluso se ha negado la legitimidad para hacerlas a los sindicatos de la ertzaintza porque de organización no tienen que hablar

exclusivamente a ustedes según dicen y lo que han hecho es imponer el plan como en tantas otras ocasiones y a pesar de que dijeron que era un plan dinámico lo que podría hacer pensar que si no funciona se puede modificar lejos de ello

porque están haciendo gala una vez más de esa actitud dialogante donde las haya señora consejera suya

y han hecho caso omiso de todas las disfunciones que los sindicatos

ha denunciado que tiene el plan como decía el objetivo del plan debiera ser la ciudadanía vasca y tener en cuenta a los agentes que deben implementarlo

está totalmente alejado tanto de la ciudadanía como de los agentes y tiene una misión puramente economicista y publicitaria

de forma precipitada y de forma improvisada y no se ha dotado de los medios suficientes cuando se puso en marcha no estaba configurada la relación de puestos de trabajo no se sabía por tanto qué funciones

que formaban parte de las distintas unidades pero aun así sin este conocimiento se hicieron desaparecer unidades

consejera un replanteamiento por lo menos introducir sus modificaciones aunque para algunos incluso sería necesario su sustitución integra

todos ellos todos criticaron el plan y pusieron de manifiesto que los cambios que este había traído la nueva estructura

usted señora consejera consideró en ese momento que las críticas de los sindicatos tenían una única razón

que se iban a celebrar era de suponer yo se lo dije entonces que una vez celebradas las elecciones sindicales

pues todo lo contrario señora consejera llegaron las elecciones sindicales y lejos de solucionarse la situación laboral

en pie de guerra todos los viernes y todos los días haciendo manifestaciones ha conseguido algo muy difícil señora consejera que es la unanimidad sindical

denunciar la nefasta gestión que está realizando en algo tan importante como es nuestra ertzaintza y es una pena señora consejera que de esto no le pueda echar la culpa el gobierno de madrid aunque todo se andará yo estoy por ver porque esta misma semana ha vuelto a hacer gala de esa sempiterna actitud lastimera y quejica de reclamación y denuncia permanente cuando lo que debieran

las disfunciones que su departamento con relación a las medidas adoptar con el terrorismo yihadista yo misma denuncie en esta cámara tratan de imputárselas al gobierno de madrid es vergonzoso señora consejera vergonzoso y absolutamente irresponsable

solo para cargar contra el gobierno central y es vergonzoso y absolutamente irresponsable que en un tema como este ponga en duda que no se trasmite la información pero como le decía

pusieron de manifiesto que esa pretensión de ganar en cercanía no se había conseguido sino que en este momento

esa cercanía se ha perdido y pusieron como ejemplo la gestión compartida que desde este grupo también se plantearon muchas dudas

en la atención ciudadana es una unificación encubierta pusieron de manifiesto los sindicatos que su objetivo era puramente económico y que lejos de mejorar el servicio se había producido un déficit del mismo y del servicio prestado a la ciudadanía con lo relativo a la investigación

y que parte de esa mejora podía venir de la formación de la formación y de dotar de más medios personales y materiales antes el sistema de investigación era setenta por ciento treinta por ciento es decir setenta por ciento atención al público treinta por ciento investigación de casos lo que hicieron fue al revés

a que hay que cambiar a los agentes de horarios y modificar las condiciones laborales con pérdidas de retribuciones pérdidas de retribuciones sí porque en muchos casos eso suponía

se ponen de acuerdo para ahorrar los gastos de desplazamiento y por supuesto los agentes de base

eso sí en el año dos mil trece sin contar con la utilización de los coches oficiales uno millón de euros gastó el departamento en dietas de los mandos

tenga que declarar en un juzgado de bilbao como imputada qué va a hacer al respecto señora consejera va a modificar el sistema de sobresueldos de los mandos siguiendo con la investigación se ha quitado de gente de atención al público

y a veces se les indica que vuelvan al día siguiente a usted le parece normal eso señora consejera le parece normal que alguien que va a denunciar un delito del que ha sido víctima con lo que ello supone se le diga no hay gente vuelva usted mañana

y además no se le da para la atención al público perdone y no se le dan herramientas para hacer la investigación con relación a la prevención

ha sido un fracaso en este momento en las comisarias tienen menos agentes

y las no uniformadas se han reducido mucho porque lo que se quería era conseguir una presencia uniformada en la calle y ello se ha hecho a costa de retirar el personal no

uniformado y que ello puede ayudar a generar una sensación de seguridad

por encima de la imagen tiene que estar la efectividad y esa efectividad en este momento muchas la ponen en dudas

uniformadas sí pero por qué porque se ven más porque se ven más porqueesa es su única obsesión la única obsesión de su departamento señora consejera la imagen la imagen y la imagen

eso por lo menos fue lo que dijeron aquí si no es cierto que me está diciendo que no es cierto dígalo usted hoy aquí y a eso sabe cómo se le llama bucear con boya

en este caso la boya la ven los delincuentes pero eso parece como le digo que le da igual porque claro la imagen y la estadística siempre la estadística de hacer

en las formas de registrar los hechos que se denuncian todo con tal de que la estadística y la imagen no se vea empeorada nos vamos a referir también a la brigada móvil que es el cuerpo

y de prevenir incidentes graves y atajar los disturbios si los hubiera

se mandan dos furgonetas es decir dieciséis agentes y en ocasiones no se manda más es verdad por motivos puramente económicos o políticos pero a veces porque no hay más por que no hay más porque la brigada móvil se está encargando en este momento de realizar los traslados de presos

comisarías en las que estaban radicadas los centros penitenciarios ahora no ahora lo hace la brigada móvil con su

lo cual supone un incremento en tiempo y supone un despropósito y después más datos al respecto desde luego los datos señalan que las críticas

en este año dos mil catorce y si todos los sindicatos critican con una unanimidad que raya la estupefacción señora consejera

sorprendida porque no sé si estaba escuchando a una parlamentaria del partido popular

que una representante del partido popular con las causas que tienen en los recortes laborales esté aquí enarbolando la bandera sindical pero bueno cosas de la vida usted lleva tiempo

y por esa vía también se ha sumado a la descalificación del plan estratégico y a exigir la retirada

al gobierno pero por lo visto le interesa más generar un estado de opinión negativo hacia la ertzaintza que reconocer que por ejemplo tenemos

nuevos aspirantes a las doscientos cincuenta plazas de la promoción número veinticinco

que están ya preparando con ilusión y que se examinarán el próximo día seis de junio chicos y chicas jóvenes que van a optar al proceso de selección para acceder a algo que para ellos y para ellas es una ilusión trabajar en la ertzaintza

ilusión que espero que el ministerio de hacienda no apague

el número de plazas y dejando en papel mojado lo que en su día acordó bilateralmente la junta de seguridad

y en más de una ocasión también ha expresado estar de acuerdo a la necesidad de mantener el número actual de ertzainas en servicio

una obligación que no debemos posponer y mucho menos eludir en vez de incidir en eslóganes sindicales asentados en el no por el no podría reconocer señora llanos como lo hace la ciudadanía en la última encuesta

que decía que el sesenta y uno por ciento de los encuestados aprueban a la ertzaintza aprueban sus formas de actuar y sus servicios en euskadi solo dos de cada cien personas sitúan la seguridad entre los tres problemas

lo que deja meridianamente claro que la percepción de seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas mejor que en el pasado o reconocer como lo han hecho incluso entidades privadas que en euskadi se vive seguro por suerte

una vez más el número de delitos y faltas ha descendido respecto a las mismas fechas de dos mil catorce y la tendencia es a la baja la tendencia se va consolidando un seis coma ocho por ciento menos de delitos y faltas que en el mismo periodo de enero a marzo de dos mil catorce apenas superamos la tasa de treinta y nueve

euskadi como le decía es un país razonablemente seguro y es justo reconocerlo y reconocer el mérito de las personas que trabajan para que eso sea así

tienen una responsabilidad y un mérito que debemos reconocer pero también hay que reconocer el valor y el desarrollo del plan estratégico para el logro

los ciudadanos y las ciudadanas lo hacen señora llanos le invito por ejemplo a que lea algunos de los testimonios de las víctimas que en el último informe del observatorio de violencia de género de bizkaia han dejado y le voy a leer textualmente la mayoría de las mujer entrevistadas realiza una valoración muy positiva

como en el proceso de seguimiento y protección y en el mismo informe otras mujeres destacan con relación a la atención recibida la calidad de la información el buen trato recibido y la protección ofrecida en el día que presentaron la denuncia

tanto a la hora de presentar la denuncia como

en ambos casos reflejan que el grado de satisfacción es elevado puntuaciones medias superiores a ocho coma cinco sobre diez valoraciones además que se mantienen en el tiempo en esas encuestas que venimos realizando desde dos mil doce dos mil trece y dos mil catorce ha hecho usted aquí referencia también a que

recientemente hemos remitido al parlamento el informe de ekinbide y la realidad es que en dos mil catorce hubo trescientos ochenta y ocho quejas un poquito más de una queja por día trescientos ochenta y ocho quejas de un total de más de ochenta y seis mil denuncias tramitadas

tenemos cuarenta y uno centros de atención al público a lo largo y ancho de la geografía de la comunidad autónoma del país vasco el dos mil catorce atendimos y registramos más de ochenta y seis mil denuncias y se quejaron del servicio

y si ese es un dato más que razonable en esa comparativa de denuncias tramitadas con queja recibidas se convierte en insignificante con relación a los cientos de miles de servicios que la ertzaintza y que los y las ertzainas ofrecen cada día

en cualquier caso sean muchas o pocas son importantes y nos sirven para mejorar las atendemos las estudiamos y nos sirven para mejorar pero alarmar innecesariamente si no hay datos objetivos señora llanos no no voy a decir que somos absolutamente ejemplares desde luego que no tenemos sentido de la autocrítica y tenemos mucho que mejorar y lo estamos haciendo y en eso trabajamos cada día evaluando cada una de las actuaciones pero utilizar esos datos para desprestigiar un servicio o todo un plan estratégico está fuera absolutamente y resulta extraño que

está haciendo bien que se están haciendo bien que el plan estratégico en cuanto actuación y transformación nació también dentro de la propia

que nació de una reflexión interna y que desde ese primer momento trabajó y sigue haciéndolo para actualizar racionalizar y adecuar las estructuras organizativas y los objetivos estratégicos a los nuevos tiempos a los tiempos que estamos viviendo hoy en términos de necesidades y exigencias de la sociedad vasca y a estas alturas

de acciones e iniciativas que ya son un hecho una realidad de realidades que gracias al trabajo diario hoy funcionan mejor que antes siento que el partido popular también en este caso se haya alineado con los agoreros

con las personas que se escudan en la descalificación global y que no quieran ver nada positivo en lo que otros vemos oportunidad para trabajar a no ser señora llanos que con esta valoración negativa del plan estratégico de la ertzaintza horizonte dos mil dieciséis también

como lo he visto que es así con las reivindicaciones económicas y laborales

es decir con la protesta contra los recortes que desde hace ya tiempo se impusieron desde el gobierno de madrid sí señora llanos desde el gobierno de madrid

usted ha llegado a decir en alguna ocasión que ha visto a la

que la ertzaintza no solamente está cuestionada por el partido popular sino también por los sindicatos estaría bien primero que no puntualice que no mezclara

de la ertzaintza los que están desarrollando el plan estratégico

y su trabajo merece la consideración de todos nosotros en segundo lugar estaría bien que no se olvidara señora llanos como ya le dicho que buena parte de esas quejas

tienen que ver precisamente con esas medidas laborales adoptadas por el propio gobierno del partido popular que parece que permanentemente se les olvida

gracias señora presidenta mire señora consejera no me ha sorprendido casi nada de lo que me ha dicho

lo de los sindicatos porque ya sé que en su departamento dicen que soy la persona interpuesta de los sindicatos en esta cámara y sé que eso procede de su propio departamento y me da exactamente igual y no me hable de los recortes porque ustedes tuvieron una sentencia que permitía

y la recurrieron si tanto les importaba esos recortes si no querían hacer esos recortes no haber recurrido la sentencia y haberla acatado pero les venía fenomenal y ustedes han ido mucho más allá de los recortes mucho más allá de lo que la legislación del estado pudiera imponer ustedes le han dado la vuelta claro

es que aquí se ha calificado por algunos como

que ha traído el caos la desorganización que es un despropósito que es un fracaso algunos le llamaron el abismo dos mil dieciséis

pero cuando todos los sindicatos lo están diciendo hubo incluso un agente que dijo que en sus treinta años

pues usted los ha hecho buenos a todos a la vez a todos a la vez y desde luego yo haré la crítica pero ustedes

es que no hacen autocrítica no venga aquí diciendo que ustedes hacen autocrítica porque no hacen ninguna porque pasó lo del foro de bilbao y para ustedes la actuación fue ejemplar y fue un auténtico despropósito y siguen diciendo que es ejemplar cómo se va a mejorar si uno autocrítica en absoluto y se lo he dicho no me ha contestado evidentemente a nada y nos plantearemos hacer la pregunta específicamente ni a lo del terrorismo yihadista ni por supuesto a qué van a hacer si van a cambiar

lo que no le consiento es que ponga en duda el compromiso de este grupo

para nada es que no tiene nada que ver nada que ver y no me venga hablando de que son ertzainas y de libre designación y puestos políticamente en sus puestos claro que

a pesar de estar como están claro que la hacen y habla de las quejas de un treinta y uno por ciento y sabe por qué no hay más

porque no se facilita precisamente que los agentes informen a los ciudadanos de cómo pueden poner una queja por eso no hay más si no habrían bastantes más porque no es normal hacerle a una persona pero si usted me llegó a decir pero si no importa nada con poner la denuncia la día siguiente lo importante es que se de conocimiento de que se ha producido un delito claro que es importante presentar la denuncia

lo que quiere es cuanto antes descargarse de esa sensación y la descarga de esa sensación se consigue poniendo la denuncia inmediatamente no volviendo al día siguiente

y eso es para estar orgulloso de verdad señora consejera eso es decir que funciona todo de maravilla y no me venga diciendo que la ertzaintza funciona por el plan horizonte dos mil dieciséis

por la profesionalidad de sus agentes porque la organización que ustedes han puesto lo ha puesto todo patas arriba que me dice de lo de la brigada móvil usted cree que es normal tener que hacer cuatrocientos kilómetros y en algunas ocasiones la sustitución

y luego además con un agravante que a veces como tampoco se puede y no se llega porque

y eso funciona de maravilla la unidad de rescate que dijeron ustedes que a partir de ahora

de mañana y de tarde porque si se producía por la noche pues mira que se rescatasen solos eso también es un planteamiento maravilloso mire señora consejera yo no frivolizo

pero es verdad que la información de lo que funciona las dan los sindicatos que por supuesto tienen derecho a hacer sus reclamaciones laborales o es que no tienen derecho a hacer sus reclamaciones laborales y económicas

que fueron a reuniones que se han realizado y pusieron de manifiesto que estaba funcionando la ertzaintza de forma absolutamente desastrosa y como usted parece

no se puede soplar y sorber al mismo tiempo definitivamente el plan estratégico de la ertzaintza horizonte dos mil dieciséis

las manos a la cabeza seguro que es mejorable y en ello estamos en cualquier caso nos ha servido para establecer una estructura

para la protección ciudadana la investigación criminal y la inteligencia

la gestión de comisarías de tamaño medio geográficamente cercanas y reducir así la carga administrativa y ganar más operativos el plan estratégico de la ertzaintza horizonte dos mil dieciséis nos ha servido para adaptar la brigada móvil dimensionarla a los nuevos tiempos a las necesidades actuales

y dotarla de nuevos y modernos elementos de protección nos ha servido para poner en marcha nuevas estructuras de investigación de casos mejorando los métodos y las formas de trabajo

y con colectivos vulnerables está siendo una herramienta eficaz para establecer nuevas líneas de actuación

de peligros emergentes como el islamismo radical asociar

su propia seguridad también forma parte de los principios formativos de la instrucción habitual

en los que participan todos han reconocido abiertamente que entre los distintos cuerpos policiales por ejemplo existentes en el estado español

donde muchas de las medidas de seguridad que se piden implantar y extender ahora a otros cuerpos eran ya habituales y esa es la realidad señora llanos partimos de una experiencia consolidada y no hay motivo alguno para que eso deje de ser así

o limite ninguna capacidad operativa que nos permita actuar como policía integral en todo lo que afecta a la seguridad de euskadi es por lo que exigimos

auxiliar o de segunda y en esto señora llanos no se puede sorber y soplar al mismo tiempo no se puede pedir más seguridad mejor gestión de la seguridad y al mismo tiempo escatimar información o impedir el acceso a los órganos de decisión a los órganos donde se comparte

todo lo que tiene que ver con la seguridad con los riesgos de inseguridad vengan de donde vengan y eso es lo que le reprochamos al partido popular

este plan estratégico está siendo eficaz a la hora de intensificar la colaboración con policías locales y coordinar información y medios

un servicio de calidad con más presencia en la calle más proclive a la comunicación y para ir elevando el grado de reconocimiento social hoy el plan estratégico de la ertzaintza horizonte dos mil dieciséis es la materialización práctica de las mejoras que le acabamos de citar

que son necesarias para ir adaptándose al día de hoy y para crecer mañana

el problema que tenemos es que tenemos una inercia y cambiar las inercias son muy difíciles es difícil y es doloroso

y no quiere hacerlo de otra eso lo dijo un representante sindical en este parlamento el plan estratégico de la ertzaintza constituye ya la ertzintza de hoy

ahora nos toca consolidarlo y reforzarlo y ese es el reto señora llanos al que no vamos a renunciar

y con el que me gustaría compartir con usted y encontrarle

le ha costado a usted llegar a la pregunta que me hizo

los diferentes aspectos de su opinión con respecto tanto a la huelga que parece que no han compartido mucho los trabajadores ni con respecto al sistema sanitario que parece que tampoco comparten mucho los ciudadanos me va a permitir que me centre

preguntado que es cuáles son las intenciones del departamento de salud en relación con la enmienda transaccional aprobada el pasado mes de octubre en esta cámara sobre la garantía y oferta de empleo de calidad en osakidetza hala ere barkatu egin beharko didazu

treinta de octubre se han añadido a los que como bien sabe aunque no le agrada está dando el gobierno en esta dirección bai testu hau onartu

hainbat urrats egin du lan arloko akordio bat lortzearren el primer punto de la transaccional decía negociar y acordar en la mesa sectorial la suficiencia de recursos humanos en osakidetza para garantizar la asistencia sanitaria universal equitativa y de calidad

incluida la convocatoria de una oferta pública de empleo precisamente señora ubera ese mismo mes de octubre

una oferta pública de empleo para el dos mil catorce y el dos mil quince un expediente de ampliación de plantilla y medidas para incrementar los nombramientos de interinidad

entonces como ahora apuestan por la estabilidad del empleo y la prueba es que la oferta que está encima de la mesa

dos mil quince y la ofertada para el dos mil dieciséis un esfuerzo que no se ha visto correspondido desde la parte sindical

que no se ha movido de posiciones maximalistas y no factibles con la ley en la mano como usted muy bien conoce

y encuentros mantenidos el último este lunes

sindicatos que quieren hablar de la ope en privado y que en la mesa sectorial rechazan la oferta aún así seguimos apostando por la calidad de la asistencia sanitaria

también le voy a recordar señora ubera dado que el primer punto la transaccional hablaba de universalidad que no oyó el comité europeo de derechos sociales

en el que destacaba violaciones específicas en la carta social europea en el estado español concluya que las prestaciones son solo adecuadas en el estado

en el campo de la universalidad como ve no lo digo yo lo dice el comité europeo de derechos sociales unibertsaltasuna zerbitzuaren kalitatea

bide argia en cuanto al segundo punto abrir las vías para un incremento de las tasas de reposición que garantice la cobertura de bajas por jubilación

tienen un límite definido desgraciadamente por legislación básica

y que además este gobierno no está de acuerdo con ella momentu honetan birjartze tasa delakoa madrilgo gobernutik aginduta dator vamos a convocar una oferta pública de empleo con las plazas que se pueden ofertar con seguridad jurídica no estamos aquí para hacer propaganda

sin interferencias ni trabas legales el gobierno

y se lo voy a decir alto y claro no vamos a correr el riesgo de iniciar un proceso que no tenga total garantía de llegar a término por muy bien que quede decir

vamos a convocar las que van a tener seguridad jurídica en cuanto al tercer punto de la enmienda la elaboración de un plan de empleo a medio o largo plazo puede decirle señora ubera

dos mil dieciséis negociado y suscrito con la representación del sindicato médico de euskadi que dado su interés por los sindicatos entiendo que no le parecerá despreciable así las necesidades de personal han sido analizadas y de hecho otra de las ofertas trasladadas a la mesa sectorial es un expediente de ampliación de plantilla

el cuarto punto recoge la recuperación del espíritu de acuerdo y consenso del año dos mil que perdió las treinta y cinco horas esto es algo que a nuestro criterio no se debe negociar específicamente para osakidetza y por lo tanto no en la mesa sectorial

creemos que debe ser para el conjunto de trabajadores de la administración

no es una cuestión sectorial y entiendo que usted no la está reclamando solo

es una cuestión que exige ser planteada con coherencia en la mesa general por otro lado como usted muy bien me ha recordado

la implantó un gobierno del partido nacionalista vasco soplaban otros vientos económicos en euskadi pero probablemente

a ese acuerdo que logramos no me cabe la menor duda sobre la puesta en marcha de medidas de fomento del empleo

y sigue abierto a la negociación pero bueno señora ubera conoce usted alguna institución ayuntamiento o diputación foral o entidad dependiente que sustituya el cien por ciento de las ausencias

dígamelo iré a hacer un estudio para ver si somos capaces de hacerlo

foral de gipuzkoa sustituyen todas las ausencias por cualquier motivo y de todos los trabajadores

una oferta muy concreta a la mesa sectorial comprometiéndose en el ámbito de atención primaria

que tenga asignado el cupo máximo de tarjetas sanitarias y en el ámbito hospitalario se han ofertado mejoras

además del personal de los servicios especiales urgencias cuidados intensivos

salas de endoscopia y hospitales de día supongo que conoce los términos de la oferta

también lo conozcan y así valoren el inmovilismo

finalmente y en alusión al sexto y último punto de la transaccional que pide analizar las situaciones de empleo eventual

las distintas situaciones de empleo eventual nuestro compromiso es continuar atendiendo las necesidades de personal

de profesionales en régimen de interinidad cubriendo las vacantes que se van produciendo hasta los correspondientes procesos periódicos de consolidación de empleo concluyo creo que he citado al menos lo esencial vuelvo a subrayar

sino de lo que hemos hechos siguiendo las recomendaciones de esta cámara para seguir avanzando y para preservar el sistema sanitario público de calidad y del que gozan los vascos y las vascas en las alusiones que me ha hecho al objeto de la huelga le diré que los mínimos terribles que

a día de hoy son los de un festivo donde no funciona ningún quirófano ninguna consulta

y usted lo conoce porque no los dicta osakidetza no se ha hecho

pero por supuesto no se ha suspendido la actividad de tarde que estaba organizada y que les corresponde a los trabajadores decidir si la quieren desempeñar o no y luego

no es insostenible lo gritan los ciudadanos y lo gritan la mayoría de trabajadores que hoy no se han sumado al conflicto pero igual hay que diferenciar entre lo que piensan los ciudadanos lo que piensan los trabajadores y lo que piensan los sindicatos eskerrik asko

yo le he dado una cita de la comisión de derechos humanos de la unión europea

la calidad y la equidad del sistema para preguntarla tenemos un termómetro que se llama ubera no sabía era una novedad yo espero que me lo juzguen los ciudadanos y en el juzgado anterior nos pusieron a nosotros vamos a ver mire

la transaccional hablaba de la calidad pero bueno cuál es su verdadera preocupación cuál es realmente su intención pero bueno si quiere hablamos de calidad de los servicios sanitarios hablamos

satisfacción de los pacientes no la suya que ya nos la dice todos los días pero la de la calle accesibilidad información trato confort de las instalaciones costes aunque a usted no le gusta

y salario dos conceptos y lo vuelvo a repetir

con el conjunto de los trabajadores de la administración vasca

una huelga exclusivamente en osakidetza a usted le parece que sí

en euskadi conoce usted algún otro servicio de salud de alguna comunidad autónoma en que se trabajen

mire en navarra en la rioja en cantabria

una semana laboral más al año y hoy están trabajando sin ningún conflicto y lo que es más curioso con los mismos sindicatos señora ubera

y no pensamos que los profesionales de osakidetza sean unos privilegiados cosa que no he dicho nunca

pero comprenden mejor que usted la situación actual y cada día dan pasos para mantener el servicio con los sindicatos y sin ellos

se puede sacar en la ope plazas más allá de la tasa de reposición con de garantías

yo creo que no al menos cuando hablamos de un gobierno responsable parece que usted

y paren la ope para todo el mundo pero no estamos por la labor y de paso no estaría mal

curiosamente como me decía esta mañana la señora roncal

respecto al desarrollo profesional se ha ofertado recuperar la carrera profesional desde octubre de dos mil quince

como usted sabe ela y lab siempre han estado en contra del modelo de desarrollo

sustituciones nos están pidiendo el cien por ciento de sustituciones para todos los puestos y desde el primer día vuelvo a repetir es cierto que la atención sanitaria tiene connotaciones especiales y diferentes

hay alguna otra administración en euskadi gobernada por su partido o por cualquier otro que sustituya al cien por ciento cualquier puesto de trabajo desde el primer día

exige este porcentaje de sustitución a las empresas que prestan los servicios dé ejemplo a ver si aprendemos podría seguir pero el tiempo da lo que da zertaz ari gara

ere hala izango da y agradecerle la pregunta en el día de hoy

la oferta en la mesa sectorial que ha sido muy importante eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako laugarren puntua

gracias de nuevo señora presidenta y buenos días también de nuevo a todos

el hospital comarcal de zalla tendría que haber estado construido ya

en este momento además el centro de salud de zalla da servicio no solo a toda la población de las encartaciones sino que también a vecinos

en el ambulatorio de zalla el consistorio en su afán por materializar la construcción de este centro cedió un solar

que recientemente ha sido recuperado por el propio ayuntamiento por incumplimiento de las

por un importe de medio millón de euros que lamentablemente y a tenor de lo que ha sucedido van a ser desaprovechados por lo menos en el corto y en el medio plazo

el abandono que sufren las encartaciones como la inexistencia de una línea de autobús que una directamente con cruces lo hicimos la semana pasada con ura y también queremos denunciarlo

a este hospital a esta dotación sanitaria por ello nos gustaría señor darpón escuchar de su boca un compromiso

para la ejecución de esta dotación ya que no lo consiguió el ayuntamiento de zalla que le propuso una declaración conjunta un cronograma

y por eso le pregunto qué plazos manejan en su departamento y si está dispuesto

para que el centro de especialidades de zalla sea una realidad

señora llanos como usted seguro conoce fue en el lejano dos mil siete cuando se planteó por primera vez la posibilidad de ampliar servicios y construir nuevo centro sanitario de zalla curiosamente por nosotros también

los cambios sociales económicos y sanitarios

y también en la comarca enkarterri algunos en sentido negativo como la crisis económica pero también los ha habido positivos

también puesta en marcha por la diputación foral de bizkaia gobernada por nosotros

y también al hospital de cruces en la que se encontraba hace ocho años la indispensable toma en consideración de estas circunstancias no supone

que renunciemos hacer realidad la mejora de las instalaciones sanitarias existentes en la comarca

la coyuntura económica y presupuestaria del gobierno no lo hacen aconsejable hoy no recuerdo yo que hubieran puesto ustedes una enmienda a los presupuestos el centro de especialidades de zalla pero puedo estar equivocado en el momento oportuno volveremos a valorar las necesidades sanitarias y la mejora de las instalaciones que precisa zalla y la comarca enkarterri la iniciativa por la que pregunta hoy señora llanos a pesar de tener importancia

no se ha ejecutado para dar paso a otras prioridades más urgentes en función de los recursos con los que cuenta este gobierno vasco y también en función de los cambios

gracias de nuevo señora presidenta mire esto no lo dicen los sindicatos lo dicen los propios trabajadores escasez de sala de espera existencia de un único ascensor que no permite el uso para camillas

ventanas cerradas con verjas que dificultan en su caso la evacuación la prestación del servicio de rehabilitación salud mental en otro edificio o falta en el espacio de almacén esto

esto es el centro de salud de zalla en este momento pero no tiene una prioridad no sabemos si a partir del veinticuatro de mayo si en lugar de ganar los independientes gana el partido nacionalista vasco entonces

y si la prioridad tiene que venir de una enmienda de este grupo no se preocupe en los presupuestos siguientes presentaremos una enmienda y como parece que eso es lo que faltaba espero que el partido nacionalista vasco la apoye y que de esa forma realmente el centro de especialidades de zalla sea una realidad no me diga que han mejorado las comunicaciones no

han mejorado pero no lo que tenían que mejorar y salvo que lo hayan puesto desde enero

los vecinos de zalla tienen que ir primero a bilbao y luego desde bilbao hasta cruces creo que eso

se podría evitar si el propio centro existiese en zalla mire sabe lo que demuestra

no quieren igual que la semana pasada la consejera tampoco se comprometió usted tampoco y además lo que demuestra es que

la sanidad vasca desde luego no brilla en todos los sitios de euskadi de la misma forma en algunos hace falta bastante para sacarle lustre y en zalla es uno de esos sitios en los que es necesario sacar

a falta de su compromiso del compromiso de su gobierno

sí estamos comprometidos nosotros no tenemos en este momento representante en zalla pero sí estamos comprometidos con los vecinos de zalla y tendrá una enmienda en el presupuesto del año dos mil dieciséis

viaje usted si le parece que el centro de zalla es del tercer mundo viaje usted porque ha visto muy poco

mire he revisado las iniciativas no solo de esta legislatura que creo que me las conozco pero también he revisado las de la pasada legislatura en el caso que nos ocupa

en la que ustedes instaran a sus socios de gobierno a acelerar la puesta en marcha de esta

por lo que celebro el interés súbito que en estas fechas esta cuestión les suscita y estoy seguro que los ciudadanos de enkarterri y de zalla lo valorarán en su justa medida mire

a día de hoy tiene la calificación de inundable se mantiene a día de hoy revise señora ubera no parece serio contradecir los criterios perdón señora llanos

que con usted seguramente la señora ubera habrá visto algo más de tercer mundo mire

fui yo no sé si usted lo conoce personalmente pero yo estuve para terminar quiero decirle de nuevo

son uno de nuestros principales objetivos pero lo que no hacemos es magia

priorizamos las necesidades las acotamos a nuestro presupuesto bajo la responsabilidad que tenemos y las vamos ejecutando pero no nos dan ataques
súbitos de interés en función del periodo y del momento eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeigarren puntua galdera cristina ruiz bujedo

sí gracias presidenta a mediados de marzo supimos por los medios de comunicación

vasca que lleva a cabo el gobierno vasco se había producido un percance concretamente un deslizamiento de terreno que generó un desnivel y afectó

aunque se anunciaba que se repararía en breve ignoro cuánto ha durado esa brevedad y si el incidente suma a los retrasos que va acumulando

por ello señora consejera le pregunto si considera que este contratiempo técnico y otros que pudieran producirse
van a retrasar el plazo de finalización de la y vasca más allá de dos mil diecinueve gracias eskerrik asko ruiz anderea erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

izan dela lehenbiziko hiruhilekoan izandako eurite handiak direla eta se va a tramitar un expediente de declaración de obra de emergencia en el que se propondrán una serie de actuaciones con el propósito de drenar toda el agua acumulada en la ladera

y por otro deprimiendo el nivel piezométrico en aras de conseguir la estabilidad

para ello planteamos la ejecución de cunetas zanjas drenantes instalación de piezómetros abiertos así como pozos de drenaje provistos de bomba y una secuencia de drenes californianos

no entendemos que haya razones para pensar que no podamos cumplir ese plazo de dos mil diecinueve eskerrik asko oregi andrea

sí señora oregi le agradezco la información y me tranquiliza su respuesta

tres representantes del colegio de geólogos del país vasco comparecieron en comisión para presentar una

en esa comparecencia una de las observaciones que hicieron los profesionales fue la importancia de anticiparse a posibles deslizamientos con especialistas de ingeniería del terreno que conocieran la singularidad geotécnica también se dijo que la dotación para

con entornos complejos y con mayor riesgos geológicos geotécnicos que en otros lugares viniendo de especialistas me pareció pertinente traer

incluso nos contaron y ahí desde luego le eximo de toda responsabilidad

el colegio de geólogos se reunió con ella y le sugirieron que aunque no era una obligación legal tratándose de

gran envergadura una investigación previa geotécnica en la fase de anteproyecto antes de licitar anticiparía riesgos que pudieran evitarse

que teniendo en cuenta este y otros deslizamientos anteriores y posibles futuros hoy vemos la importancia

y dinero en esta ocasión ha sido un desnivel y un poste de electricidad el año pasado un derrumbamiento provocó un socavón en el túnel de anoeta

no dudo de la imposibilidad de evitar incidencias al cien por ciento pero lejos de asumirlo como algo habitual igual hay que reconocer
que los geólogos tenían razón y ya no sé si hoy tiene remedio pero en cualquier caso su respuesta me tranquiliza gracias eskerrik asko

me alegro de que le hay tranquilizado mi respuesta quiero también hacer hincapié en la particular

pluviometría que hemos tenido durante este invierno todo este invierno

eso incide directamente en la inestabilidad de los terrenos en la inestabilidad de las laderas por acumulación de agua por insisto esa elevada que hemos sufrido en el pasado mes de febrero tuvimos

de índices pluviométricos que hicieron que el terreno tuviera elevados niveles piezométricos bandas de humedad rezumes de agua con carácter generalizado

a todos los que estamos o bien gestionando obras públicas o bien construyendo obras públicas porque en todas y cada una de las obras públicas

análisis o catas o estudios geológicos

han ocurrido insisto en que en el caso concreto que afecta a este tramo de tolosa

no entendemos que hemos entrado en un camino crítico por estas dificultades que como le he explicado en la primera respuesta vamos resolviéndolas apoyándonos en los estudios y en los análisis de los especialistas entre otros geólogos

de gran calidad en esta comunidad autónoma y también dentro de

necesidad de hacer estudios geológicos comparto totalmente hay que hacer estudios geológicos necesarios y todos los que sean necesarios

que hagan falta para hacer una infraestructura de este calado así se ha hecho y así se ha hecho

y así se hace en todas las obras que tenemos que hacer los estudios geológicos están ahí si son muchos pocos demasiados insuficientes

que vaya a debatir ahora no tengo los datos concretos de los estudios geológicos que se han hecho

quizá con la respuesta de la anterior me tendría que dar por satisfecha pero en cualquier caso se la voy a formular porque el caso es que las obras del tramo hernani astigarraga del tren de alta velocidad están paralizadas

administrativo al parecer si esta paralización continúa en el tiempo se corre un serio riesgo de que esta infraestructura no se finalice en los plazos comprometidos por eso le vuelvo a preguntar para que me quede más tranquila aún si cabe
si existe voluntad política y actúa el gobierno vasco en consecuencia para finalizar la y vasca en dos mil diecinueve gracias eskerrik asko ruiz andrea erantzuteko

autorizaciones seguiremos adelante con esa parte de la obra en cualquier caso también en este caso tengo que decirle que no
ante un retraso que nos suponga un camino crítico para finalizar antes de dos mil diecinueve eskerrik asko oregi andrea ruiz andrea zurea da hitza

gracias presidenta señora oregi en el último informe trimestral del treinta y uno de marzo de

la información que se daba en ese documento que aparece sobre el objeto de mi pregunta dice

que con fecha quince de enero por resolución del director de servicios del departamento se acuerda la suspensión temporal de las obras a fecha de quince de enero fecha de suspensión el volumen de obra ejecutado es dieciocho coma cincuenta por ciento

y que en el mes de febrero lo que usted nos acaba de contar se ha tramitado solicitud de autorización para

efectivamente es un tema administrativo lo que ocurre pero me llama la atención y por eso mi pregunta situación administrativa que afecta al gobierno vasco al gobierno central

ustedes interpreten de la manera menos favorable para la diligencia de las obras que ustedes acometen y sin embargo que el gobierno central interprete que la continuidad de la obra no se debiera ver afectada ni paralizada

mucha prisa y el partido nacionalista vasco que ha emplazado de manera

por eso digo que ante una misma situación administrativa quienes estaríamos mas interesados en que sea favorable a nosotros

no los que mas trabas pero digamos los mas garantistas frente a los otros actores que también intervienen en esta situación

a veces parece que el compromiso del gobierno de españa no digo a todo el mundo

entre en vigor en dos mil diecinueve el tren de alta velocidad en el país vasco

que incluso a neutralizado la labor de oposición del partido nacionalista vasco

con sus declaraciones que hizo en prensa de que es una buena noticia es posible también me quedo con las respuestas que nos ha dado ahora y espero que usted trabaje para que la realidad lejos de estropear haga de esa noticia
un buen titular dentro de cuatro años eskerrik asko ruiz anderera

bai eskerrik asko efectivamente señora ruiz trabajamos para hacer las obras de la manera mas eficiente más eficaz más profesional y con todas la garantías que sean necesarias para

con seguridad y diligencia no intentamos correr

y cuando hemos venido reclamando las diferentes cuestiones que afortunadamente se han visto atendidas con la puesta en marcha de la licitación de los tramos que faltaban

es que llevamos ya muchos años de retraso y estaban planificadas unas obras de una manera y estábamos viendo que no se daban los pasos necesarios para que eso llegara a buen puerto y por eso insistíamos en que queríamos esa planificación como usted bien sabe pero correr no

más de lo que esté establecido en los planes de obras las obras tienen sus ritmos hay que respetarlos y tampoco pretendemos correr tótem dos mil veinte

esperamos que así sea y desde luego por nuestra parte no vemos dificultades

pero no vemos que por nuestra parte haya ningún problema en la parte que nosotros gestionamos para que eso sea así espero que por parte del ministerio de fomento

tengo que decirle que hay una cosa que sí me preocupa que es la tramitación de los modificados y si usted puede echarnos una mano en madrid

los modificados se deben de aprobar con un máximo de seis más ocho meses desde que se proponen españa está tardando veinte meses treinta meses en aprobar un modificado eso sí es una cuestión crítica eskerrik asko